en el listado de lugares de importancia comunitaria para la conformación de la red ecológica europea red natura dos mil

adoptó el acuerdo de inicial procedimiento de la elaboración del correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales de conformidad con las determinaciones de la ley de conservación de naturaleza de euskadi

como cualquier procedimiento administrativo debe configurarse como uno de los instrumentos posibilitadores del cumplimiento del deber de una buena administración como un factor que potencia la posibilidad de obtener una decisión del gobierno de calidad

que cuando decida lo haga para servir de la mejor manera posible a los intereses generales que haga un análisis ponderado de los hechos e intereses que pivotan en torno a esta decisión

debe ser la consecuencia del resultado de la participación de los agentes públicos y privados también de los acuerdos entre todas las administraciones afectadas y la decisión de la figura de protección más adecuada le corresponde al gobierno en este caso a su departamento

acordó informar favorablemente la propuesta de su departamento de declarar los montes de vitoria como zona de especial conservación de la naturaleza

se ha salido en tromba contra esta decisión y vienen afirmando no sabemos

que con esta decisión se está desprotegiendo los montes de vitoria nos dicen que se va a permitir la utilización de la técnica del fracking que se va a posibilitar la colocación de línea de alta tensión

que se va a facilitar la expansión urbanística la construcción de carreteras

y todo ello sin hacer referencia a aquellas otras opiniones de algunos que se autodenominan ecologistas

cuál va a ser el sistema de protección ambiental que propone su departamento para los montes de vitoria

natura bi mila sarea gure legedian por todo ello este gobierno considera más oportuno y efectivo para la conservación de los indudables valores de ese espacio

tanto los destinados a la conservación de la biodiversidad y sus elementos como otros de carácter sectorial aprobar

y continuar trabajando con poblaciones locales y titulares de terrenos

a siguientes periodos de programación europea la red natura dos mil constituye un instrumento

su origen como saben es la directiva hábitats del noventa y dos relativa a la conservación de los hábitats y de la flora y de la fauna a través de esta directiva

afectando al dieciocho coma tres por ciento del territorio europeo tal y como se recoge en las páginas oficiales de la unión europea también

esta red es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza de la unión como tal se recoge en el primer punto de la estrategia de biodiversidad europea asimismo es un factor determinante para todos los programas de financiación europea

en euskadi aproximadamente el veinte por ciento del territorio está incluido en la red natura dos mil la conforman lugares como ordunte txingudi

jaizkibel montes alto de vitoria entzia sierra salvada todos ellos lugares en objeto central de la política comunitaria de conservación de la naturaleza superando las estrategias tradicionales de actuación sobre especies aisladas por tanto desde nuestro gobierno
reafirmarnos en una política de espacios naturales integrada en el marco europeo de protección besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

edo izan beste edozein ordezkarirekin voy a seguir practicando en todas aquellas reuniones que me permitan

y de futuro para euskadi especialmente en este momento de cambio todo paso que da el lehendakari es en defensa de los derechos de la sociedad vasca

todo lo contrario considero que es imprescindible para defender nuestros planteamientos y tratar de acordarlos para lograr convertirlos en realidad eskerrik asko

de su grupo parlamentario hablan conmigo

de la misma manera que si yo hablo con don felipe sexto no creo que esté hablando de rendir pleitesía cuando estoy planteando

el sábado pasado lehendakari la mayoría de los vecinos del barrio de usánsolo

se pronunció mayoritariamente a favor de convertirse en municipio independiente

sucede al de hace un año en el barrio donostiarra de igueldo suspendido hoy cautelarmente por el tribunal superior de justicia a instancias del ayuntamiento de donosti

como el del barrio de itziar perteneciente a deba es la extensión natural del derecho a decidir si se invoca este supuesto derecho para una comunidad autónoma por qué no para un municipio para un barrio que considera tener identidad propia se trata

de una dinámica que entendemos que va en contra del signo de los tiempos mientras en muchos países de europa y del mundo se abordan procesos de racionalización de simplificación administrativa propiciando mediante fusiones de municipios la creación de entidades municipales con una población adecuada para hacerlo sostenibles y para mejor prestación de servicios

se abre un proceso de segregaciones que se basa no en la viabilidad económica

sino en razones de identidad y de territorio por eso le pregunto cuál es el criterio político del gobierno y el suyo propio sobre la segregación de municipios en euskadi en relación a la conveniencia de racionalizar la prestación de servicios

bien señor erkoreka yo no le he solicitado que me recuerde de quién es la competencia para autorizar la segregación o fusión de municipios sabemos que está en manos de los territorios
y ya sabemos también que los árboles de una foralidad mal entendida probablemente no nos deje ver a algunos el bosque del interés común de euskadi yo le he pedido el criterio político

que tiene que mirar entiendo por el conjunto de euskadi y en esta cámara que es el parlamento de todo el país vasco y que entiendo que debe tener también una visión común del conjunto de la comunidad autónoma entre otras cosas porque las normas forales se refieren a las demarcaciones territoriales de los municipios de provincia

que nada dice por ejemplo de la agregación de municipios contiguos pertenecientes a territorios diferentes y no parece razonable que en un pequeño país como el nuestro

ni parece coherente que carezcan de una opinión clara sobre la racionalidad de mantener doscientos cincuenta y uno ayuntamientos de los cuales casi la mitad

a ofrecer todos los servicios posibles con un coste a veces inasumible vamos a abordar aquí ahora la tramitación de la ley municipal

el texto de esta ley que ustedes nos han remitido está huérfano de toda referencia a la racionalización del mapa municipal mientras este es un proceso vivo en muchos países al que supongo que queremos parecernos no lo tome como un reproche señor erkoreka tómelo como una invitación

para abordar también este debate pendiente con la mente abierta con criterios de racionalidad creyéndose de verdad que los municipios son instituciones tan respetables como el gobierno

tutelados y le invito a que esta ley marque el camino en la tarea pendiente de la revisión y modernización de nuestra ineficiente arquitectura institucional una tarea
necesaria a la que ya le anuncio que el partido socialista no va a renunciar eskerrik asko pastor jauna erkoreka jauna zurea da hitza

hace unas semanas señor lehendakari algunas radios vascas emitían unas

el locutor decía la mayoría de los vascos y vascas creemos que la sanidad la educación o la vivienda son derechos universales

sin embargo cada vez más personas piensan que los inmigrante no deberíamos tener un acceso igualitario a las ayudas o a los servicios sociales y tú qué crees volvía otra vez el locutor

están en juego los derechos de todas las personas y nuestra dignidad como pueblo gobierno vasco compromiso con las personas afortunadamente esta vez sí firmaba la cuña publicitaria la pregunta señor consejero es en serio cada vez más personas en euskadi cuestionan la solidaridad de los vascos hacía aquellos más necesitados usted cree esto es euskadi hoy menos insolidario quiénes son los que se suman

sémper permítame que comience leyéndole el artículo primero de la declaración universal de los derechos humanos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y el articulo segundo que dice toda personas tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza color sexo idioma religión opinión política o de cualquier otra índole

en la que usted ha sustanciado por escrito lo que pueda ser mi intervención y este es el objetivo el que he mencionado el de la campaña todas las personas tenemos la misma dignidad

explicó que la campaña se presentó en comisión

por lo que usted denuncia que es una campaña para pagar con dinero público publicidad engañosa y partidista usted lo formula así en la pregunta señor sémper ajústese también a lo que es su fundamento en la pregunta planteada por escrito

que los mensajes se contrastaron con ikuspegiak y la universidad

se publicó la convocatoria y se pospuso la emisión para no coincidir con las elecciones europeas que en junio la comisión interdepartamental del gobierno aprobó la campaña

y personas señor sémper es falso además de que permítame decírselo pretencioso solo ustedes has visto engaño y partidismos en todo este proceso

ni en ikuspegiak nadie en la universidad ni en ninguna agencia o medio de comunicación nadie en la comisión interdepartamental del gobierno ha encontrado tendenciosa o partidista esta campaña de sensibilización social la razón es muy sencilla la campaña es respetuosa e integradora sus objetivos están para mí desde luego muy por encima de la polémica que se ha pretendido alimentar en todos estos últimos meses eskerrik asko

como usted lo sabe señor lehendakari el grupo parlamentario popular el partido popular en general se adhiere también a la declaración universal de derechos humanos desde el primer artículo hasta el último y eso usted

vamos a intentar profundizar un poco más de acuerdo

pero vamos a pensar que es casualidad alguien podría pensar que coincidiendo en un momento político

utilizaron frases digamos gruesas insultos contra el alcalde de vitoria y contra el diputado general en relación a una denuncia

y también sobre la necesidad de mejorarla herramienta la rgi

esta campaña se emitió por las cuñas alguien podría pensar que es casualidad o no

y destacados miembros de su gobierno arremetían con dureza contra el alcalde de vitoria y contra el diputado general en relación a su posición sobre la necesidad de modificar

para que no falle para que no haya fraude para modernizar esa herramienta

es casualidad podría pensar eso o no

para arremeter también con dinero público contra el alcalde de vitoria y contra el diputado general

que usted pudiera despejar esta duda usted cree que el alcalde de vitoria usted cree que el diputado general de álava

no quiere que todas las personas tengan acceso como dice la cuña a una sanidad a una educación o a una vivienda universal usted cree que el alcalde de vitoria y que

de álava y que el partido popular vasco es un partido que no cree en que todas las personas deben de tener acceso igualitario a las ayudas o servicios sociales

para que aquellos que creen que esta campaña coincidió no de manera casual con esa polémica con esos insultos de miembros de su partido con esos insultos de miembros de su gobierno hacia el alcalde

porque sería importante también y despejaría una vez más

esa duda sobre si el gobierno vasco ha utilizado una campaña pública para hacer partidismo

y contra el diputado general muchas gracias eskerrik asko sémper jauna lehendakari jauna zurea da hitza

la campaña se presentó en comisión ante este parlamento hace más de un año señor sémper que los mensajes se contrastaron con ikuspegiak y la universidad que en febrero de este año se publicó la convocatoria y se pospuso la emisión para no coincidir con las elecciones europeas usted lo sabe señor sémper

la comisión interdepartamental del gobierno aprobó la campaña y que se difundió en el mes de septiembre los únicos que tienen dudas son ustedes señor sémper los únicos que tienen dudas y que pretenden arrimar

de una pretendida polémica en acusación además al alcalde de vitoria gasteiz o al diputado general de araba poniendo en boca de personas

lo que no es cierto como se puede demostrar de las transcripciones de las entrevistas publicadas

y presidente del partido nacionalista vasco en araba sí señor sémper sabe que usted

a este caso concreto en la acusación con respecto al alcalde de vitoria mire los mensajes de la campaña inciden en la idea de que la dignidad de las personas está por encima

yo me alegro de que también el partido popular suscriba esto obviamente por supuesto que me alegro como representantes institucionales nos corresponde unirnos

y proclamar que estamos a favor de la igualdad de las personas

a favor de la solidaridad y contra la exclusión y esto es lo que el gobierno vasco dice y hace señor sémper ni publicidad engañosa ni partidismo
hay campañas que suman hay campañas que dividen la campaña del gobierno suma eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señora consejera

e i te be dos mil trece dos mil dieciséis e i te be se compromete a contribuir activamente a la sensibilización social por la deslegitimación del terrorismo y a difundir y a promover valores cívicos de tolerancia libertad

el artículo veintisiete del estatuto de redacción de las empresas del ente dice que se tratará con especial rigor respeto y sensibilidad a todas las víctimas de cualquier acción

yo le pregunto si considera compatible utilizar la expresión presos políticos para referirse a los presos de la banda terrorista eta con la deslegitimación del terrorismo que debe

el plan estratégico de e i te be dos mil trece dos mil dieciséis y el estatuto de redacción de la empresa del ente recogen el compromiso de e i te be de contribuir a la sensibilización social por la deslegitimación

y de tratar con especial rigor respeto y sensibilidad a todas las víctimas de cualquier acción terrorista efectivamente señor maneiro dicho compromiso está recogido en los citados documentos porque el ente público e i te be está altamente comprometido con la defensa de los valores de la democracia la paz y la convivencia zentzu horretan informazioa tratatzeko arauak

qué hacemos entonces con presentadores que

la expresión presos políticos para referirse a los presos de eta qué es lo que hacemos con ellos qué es lo que usted les va a decir van a seguir en su puesto o van a tomar

señora consejera tenemos una e i te be que no cumple los principios de pluralidad neutralidad veracidad y profesionalidad tenemos una e i te be que está al servicio del nacionalismo del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco tenemos una e i te be que cada vez la ve menos gente sus índices de audiencia siguen reduciéndose

donde determinados presentadores o moderadores además de servir al nacionalismo llaman presos políticos a los presos de eta un simple ejemplo hace aproximadamente dos semanas en el programa seis argazkitan

el presentador del propio programa le pregunta al señor iñaki esnaola por los presos políticos es decir tenemos a un presentador

y esto es absolutamente inaceptable es un simple ejemplo pero evidentemente no podemos descartar que se hayan producido últimamente otros casos en todo caso un simple caso a nosotros nos parece

inaceptable la actitud del presentador que llama presos políticos

presentador no puede seguir en su puesto efectivamente hay que recordarlo los presos de eta no son presos políticos no hay presos políticos

y los presos de eta están presos por delitos perfectamente establecidos en el código penal

que esta actitud nos parece absolutamente inaceptable no sé si usted tenía conocimiento de lo que ocurrió en ese programa no sé si usted lo vio yo sí lo vi me parece absolutamente

a este presentador no podemos admitir que se utilice la expresión presos políticos para denominar a los presos de eta absolutamente inaceptable por lo tanto dígale a la señora iturbe que tome medidas

que tiene que irse cuanto antes que dimita porque no tiene el apoyo de esta cámara pero en todo caso tome medidas en relación a ese presentador localice el programa véalo escúchelo y a continuación tome medidas porque no estamos dispuestos a aceptar que desde una televisión pública vasca

realizan su labor bajo un fuerte compromiso de mantener la imparcialidad respetar la dignidad e intimidad de las víctimas el recuerdo de su memoria y daño causado y evitar la incitación o justificación de la violencia y cuidan de manera minuciosa el éxito utilizado primando siempre

y adjetivación el uso del lenguaje refleja la línea editorial de e i te be señor maneiro y este es sin duda una línea comprometida con los valores

gracias señora presidenta muy buenos días a todos lehendakari el objeto de esta interpelación no es un asunto menor y sé que no es un tema nuevo sobre el que se vaya a tratar

se trata del anuncio de su gobierno en el mes de agosto del fin de las ayudas a la conciliación

esto no hace sino corroborar que estamos ante un problema estructural que se va a agudizar en los próximos años si no hacemos nada si seguimos desplegando las mismas políticas sociales

cómo afrontar con garantías una política de apoyo a las familias de verdad

el ararteko presentó un informe extraordinario sobre políticas de apoyo a las familias en euskadi que viene a ratificar y a poner en alerta a los poderes públicos y a los agentes sociales

el progresivo envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional que asegure una continuidad en el estado de bienestar tal y como lo hemos conocido hasta ahora como una de sus graves consecuencias euskadi está inmersa en un proceso continuo de envejecimiento de su población y aunque desde hace tres décadas la población en volumen no ha experimentado varios cambios

a variado sustancialmente hacia los grupos de mayor edad las previsiones indican que en el año dos mil veinticinco en euskadi habrá

es decir el veinticinco por ciento de la población será mayor

fruto de ello euskadi se configura como una de las regiones del mundo con las tasas de envejecimiento más elevadas una tendencia que muy probablemente se va a mantener en el futuro si no lo corregimos si no actuamos con la determinación que exige esta previsión con esta tendencia es impredecible a todas esasfamilias o es en este sentido mejor dicho imprescindible incentivar a todas esas familias que deseando tener hijos hoy no los tienen

por la ausencia de conciliación de la vida familiar y laboral directamente o por dificultades económicas deciden no tenerlos tanto el parlamento europeo como el consejo de europa y distintos organismos y entidades de ámbito estatal y autonómico han publicado diversos informes

del problema de forma inaplazable todos los textos coinciden en que las medidas deben ser transversales y que no basta con abordarlas por separado

demografía y conciliación de la vida familiar y laboral en estas recomendaciones que coinciden en buena parte con el informe del ararteko

económico laboral y fiscal los datos por inversión

son del uno por ciento en el resto de españa del uno coma cinco por ciento cuando la media de los países de la unión europea es del dos por ciento y otros países como alemania noruega o francia están muy por encima de estas cifras

deben ser transversales y si bien son importantes e imprescindibles las ayudas económicas directas a las familias estas de nada sirven si no se complementan con otras medidas como el aumento de las semanas de baja por maternidad

sea una realidad y que los progenitores no tengan que renunciar a parte de su actividad profesional como la racionalización de los horarios en las empresas y en los comercios

se tiene los mecanismos y debemos poner en marcha es decir hay competencias hay facultades para poner de forma inmediata medidas que fomenten la conciliación

a aquellas empresas que tengan iniciativas que vayan en esta dirección por ejemplo mientras tanto la realidad es que hoy hay miles de familias en euskadi que se han quedado sin las ayudas que esperaban porque no hay dinero según ustedes y cabe preguntarse lehendakari

retroactivo se dan cuenta del importante trastorno que este anuncio en agosto ocasionó a aquellos padres especialmente madres que ya no pueden recuperar su jornada a tiempo completo teniendo en cuenta que se han dejado de atender las solicitudes

serán suficientes los treinta millónes previstos para el próximo ejercicio cree que ese montante es la demostración de que este gobierno asume como prioritaria

y que por tanto este gobierno prioriza una política de fomento de la natalidad en euskadi porque le recuerdo que al mismo tiempo este gobierno

y ahora se plantea según nos dicen abrir una reflexión para vincular estas ayudas a la renta y patrimonio de las familias

la creación de nuevos impuestos mientras tanto el tamaño medio de las familias vascas se viene reduciendo de forma constante desde hace más de veinte años habiéndose llegado al punto de que actualmente existen más personas mayores de sesenta y cinco años que menores de veinte la tasa de la natalidad en euskadi

una de las más bajas de toda la unión europea si no asumimos la profunda transformación social que está aflorando nuestro sistema de bienestar

teniendo en cuenta que existe una importante distancia entre las políticas de apoyo a las familias en euskadi y las políticas más avanzadas y protectoras que se están promoviendo en otros países le pregunto lehendakari cuáles son los planes para desarrollar en euskadi desde ahora una política integral de apoyo a la natalidad y a las familias con hijos e hijas

andrea lehendakari legebiltzarkideok quiroga andrea durante el siglo pasado y lo que llevamos de este hemos asistido en euskadi al igual que en el conjunto de los países desarrollados a dos transiciones demográficas la primera la que vino determinada por el paso de las sociedades preindustriales a las industriales y que supuso el paso de la existencia de altas tasas de mortalidad fecundidad a un enorme descenso de ambas la segunda transición la actual la que se observa desde los años sesenta en las sociedades postindustriales europeas

juvenil han sido pospuestos así el momento de la emancipación familiar de la entrada en la primera unión del primer matrimonio y de la paternidad o maternidad se ha producido también una revolución silenciosa protagonizada por las mujeres y su acceso a la participación social plena lo que ha generado efectos colaterales como la caída de la fecundidad el retraso en la edad del emparejamiento y la fecundidad a esto

o en el cuidado de personas dependientes dentro de las familias la responsabilidad sigue recayendo aún mayoritariamente en la mujer y de forma más intensa

el resultado es que las mujeres que buscan estrategias de conciliación de la vida laboral y familiar se ven abocadas a abandonar el trabajo remunerado o a reducirlo a reducir el número de hijos o a no tenerlos

para el servicio doméstico o no remuneradas familiares

este conjunto de obstáculos explican en parte la muy baja fecundidad y la culpabilización implícita de la mujer por este hecho así como la baja presencia de las mujeres en el mercado laboral

este es el escenario demográfico y sociológico en el que nos encontramos en estos momento en euskadi agravado por la crisis económica

en estos últimos años tanto en euskadi como en el estado español las tasas de natalidad

se fueron recuperando hasta alcanzar en dos mil ocho

de los últimos años sin embargo en euskadi y más claramente en el conjunto del estado español la tasa de natalidad ha vuelto a reducirse llegando a los niveles de dos mil dos es la evidencia de que la caída en las tasas de natalidad está a nuestro juicio muy vinculada al ciclo económico la causa fundamental de la baja fecundidad está relacionada con las condiciones que favorecen u obstaculizan el nacimiento

y también de los siguientes porque los problemas de conciliación relativamente limitados con un único hijo o hija aumentan de forma decisiva con dos y más

como medio esencial para reducir los costes de oportunidad de la maternidad con un cuidado de calidad que no expulse a las madres de ingresos bajos del mercado de empleo

con ayudas a los ingresos a través de subsidios familiares se supone que cada hijo suplementario comporta un aumento del veinte por ciento

la baja natalidad es por lo tanto consecuencia de complejos cambios sociales

que afectan con diferentes matices al conjunto de los países de nuestro entorno llegados a este punto entendemos que las políticas destinadas al apoyo a la natalidad

y que los ámbitos de actuación abarcan prácticamente toda la acción de gobierno de este y del resto de instituciones promoción del empleo de calidad

horarios laborales que faciliten conciliación ayudas a la conciliación permisos de paternidad maternidad todo lo que afecte a la vida de las personas y las familias a sus perspectivas de futuro tiene incidencia a la decisión de las parejas

sobre el momento de afrontar la paternidad y la maternidad y también sobre el número de hijos e hijas que desean tener la posibilidad de la conciliación no es algo que competa únicamente a las políticas sociales sino que estas deben tener condiciones que faciliten aquella tan responsable de la conciliación es el mundo empresarial y sindical

nosotros hemos iniciado como usted ha reconocido un proceso de reflexión sobre esta cuestión un proceso de reflexión que entendemos tiene que ir más allá de la mera provisión presupuestaria de una determinada ayuda económica a la familia en función del número de hijos e hijas

pero debe ir más allá las ayudas económicas son siempre bienvenidas pero hay que evaluar su efecto si es socialmente más rentable invertir en todas las familias por igual

si es más rentable facilitar ayudas a la conciliación que ayudas por hijos o hijas por ejemplo el modelo de gasto en prestaciones económicas de apoyo a las familias vigente en euskadi

un nivel de gasto menor que el registrado en los países de la unión europea de nuestro entorno aunque las familias de rentas bajas sí reciben un nivel de protección homologable a esos países la situación en el conjunto del estado es más deficitaria

equivaldría en españa al dos coma dos por ciento del salario medio la más baja de los países del entorno tales como irlanda reino unido francia bélgica alemania o italia sin embargo la situación en nuestra comunidad puede considerarse intermedia puesto que la suma de las ayudas recibidas por una familia de estas características equivaldría al dieciocho coma ocho por ciento del salario medio que se está utilizando como indicador

de países como irlanda reino unido o alemania pero estaría en la línea de francia y por encima de bélgica o de italia

no se debe solo a las políticas familiares sino al resto de sistemas como la garantía de ingresos por ejemplo el diferencial de euskadi con europa

familiares y a las políticas de apoyo a la infancia se debe no tanto a que gastemos menos en protección social

que también sino a que este gasto está mucho menos orientado

a la protección de las familias con hijos e hijas a cargo eskerrik asko aburto jauna erantzuteko

gracias señora presidenta bien yo había preguntado a este gobierno qué piensa hacer porque para

tenemos el informe del ararteko una descripción de la situación esa ya la sabemos

qué van a hacer y me preocupa que no tengan claro qué van a hacer mire esta misma semana hemos recibido una respuesta de su departamento señor aburto

nuestro grupo la primera cuántas solicitudes no van a ser atendidas en el ejercicio dos mil catorce por falta de dotación presupuestaria son solicitudes

o necesitan que una persona les ayude en el cuidado o de personas dependientes la respuesta ha sido la siguiente el número de personas que cumplen los requisitos para poder acogerse a esas ayudas es de dieciséis mil novecientos cincuenta y ocho

solicitaron esa ayuda para este año dos mil catorce

mujeres mujeres ayer teníamos un debate aquí en este parlamento

este gobierno no les ayuda porque cuando ya han tomado la decisión

este gobierno les da la espalda eso sí nos dicen

van a recibir ese dinero el año que viene es decir con cargo de dos mil quince por tanto esos treinta millónes que dicen que van a dedicar se les van a volver a acabar en el mes de febrero porque no va a llegar esa ayuda

que haya solicitado esa ayuda y que no la vaya a recibir sino que ya en el año dos mil trece

sin recibir esa ayuda creo que deben dar una explicación más allá de una descripción de la situación

lo que más me preocupa de esto es que hay una falta de voluntad

si ustedes apoyan si ustedes tienen como prioridad la conciliación de la vida familiar y laboral si ustedes creen que efectivamente hay que apoyar a las mujeres con políticas de verdad como esta

sabemos que el crédito se había acabado en el mes de febrero pero ustedes saben que es una cuestión de voluntad política que se hubiera dotado de presupuesto suficiente para atender a estas dieciséis mil mujeres porque con una ampliación de crédito

y es cuestión de voluntad política este gobierno apuesta o no por tener medidas de conciliación de la vida familiar y laboral o no esa es la pregunta no puede lanzar balones fuera no puede decir que el sistema y que las cosas están cambiando no ustedes tienen competencias tienen una serie de medidas que han puesto en marcha que generan una serie de demandas dieciseis mil mujeres han solicitado

se les ha dejado tiradas usted se ha preguntado cuántas mujeres de esas

entera eso es lo que cabe preguntarse en este momento

consejero lo que tenemos bien claro es que después de escuchar en esta interpelación y esperaremos a ese segundo turno pero lo que tenemos claro es que no podemos

de que este gobierno decida según su voluntad si estas ayudas se van a hacer efectivas o no por eso le anuncio que no vamos a presentar una moción

tenga estas ayudas como un derecho como un reconocimiento como un derecho exactamente como la renta de garantía de ingresos porque si no estarán al albur de que este gobierno decida

todas esas solicitudes por eso señor consejero señor lehendakari más allá de las palabras queremos hechos y los hechos están ahí y se demuestran de esta manera teniendo los recursos suficientes
para la conciliación de la vida familiar y laboral eskerrik asko quiroga andrea aburto jauna zurea da hitza

maternidad y a la paternidad seguramente

créame pero no nos haga el debate sobre la voluntad política este gobierno anunció por activa y por pasiva que no iba a gastar el dinero que no tenía usted sabe que por lo tanto no es un problema de voluntad política sino de recursos

a todos y cada uno de los compromisos y como usted bien dice en todo caso será una modificación legal la que tenga que anunciar o decir que estas ayudas son derechos subjetivo porque hoy por hoy no lo son

a pesar de eso y a pesar de que usted mezcla un doble debate que

una la del corto plazo qué hacer con las ayudas a la conciliación y si respondemos o no y donde hemos dicho hemos tenido problemas en el dos mil catorce

y en el dos mil quince los vamos a solventar y vamos a cumplir con esa perspectiva además de eso

y no hay que mezclar esas dos cuestiones por lo tanto qué va a hacer este gobierno respecto a la primera parte en el dos mil quince mantener el decreto

hacer una reflexión una reflexión sabe para qué señor quiroga para que no pase esto del abc de ayer

las leyes de apoyo a la maternidad papel mojado ocho gobiernos autonómicos casi todos del pp han aprobado en los últimos años la iniciativa legislativa popular redmadre da buena imagen pero después no ha habido voluntad política

y no está funcionando eso es lo que está ocurriendo en el estado

la única comunidad que mantiene las ayudas a la conciliación lo sabe usted claro que no hemos pagado lo sabe usted y sabe también

que este gobierno tiene el compromiso de pagar en el mes de enero y sabe usted también

este gobierno no ha incumplido ninguna ley señora quiroga no ha incumplido ninguna ley y usted lo sabe

yo lo entiendo este gobierno ha cumplido todos y cada uno de sus compromisos en esta materia y lo que ha dicho es que va a pagar en el dos mil quince

y además estamos diciendo que hay que hacer una reflexión a largo plazo y que este gobierno la va a hacer

porque existe literatura suficiente porque existe preocupación suficiente

y porque es necesario abordarlo con la mayor urgencia posible porque está el envejecimiento de la población como usted ha reconocido una cuestión enormemente preocupante no solo para este gobierno sino para el conjunto de los gobiernos de europa algunas orientaciones que le puedo adelantar

esas reflexiones y que se proponen ya en diversos ámbitos mantener el esfuerzo

en el ámbito de la atención infantil mantener el esfuerzo inversor

y reforzar muy particularmente los programas complementarios o compensatorios orientados a aquel alumno alumnado más desfavorecido en el marco

reflexionar también sobre el modelo de protección económica que se ofrece a las familias en euskadi considerando de forma integral las diferentes prestaciones y ayudas

resulta a nuestro modo de ver imprescindible una reorientación más profunda del modelo de protección social

que tenga en cuenta fundamentalmente la necesidad de invertir en la infancia y de tomar medidas que reduzcan el peso de la herencia social

gracias presidenta lehendakari mi grupo está muy sorprendido

ha trascendido que usted pidió o reclamó un nuevo modelo de relación de euskadi con el resto del estado según la versión conocida y que no procede de la casa real usted ofreció al monarca detalles de ese llamado nuevo estatus y aquí lehendakari es donde viene nuestra sorpresa

en términos de petición o reclamación como si el rey estuviera en condiciones de aceptarlo

a ustedes que de boquilla se manifiestan antimonárquicos en el fondo les sigue poniendo y el rey reina pero no gobierna y en consecuencia no puede responder ni a peticiones ni a reclamaciones de ningún tipo pero nos ha sorprendido especialmente porque al parecer anticipó al jefe del estado contenidos de ese nuevo modelo de relación que no han sido ni debatidos en este parlamento usted quiso residenciar ese debate aquí en este parlamento usted personalmente y su grupo pactó con el nuestro las condiciones de la ponencia de autogobierno evaluar los logros y el estado actual del desarrollo estatutario y desde el máximo consenso acordar las bases para su actualización y los trabajos de la ponencia como usted sabe perfectamente

por lo que no están definidas esas bases para actualizar el autogobierno y cómo se explica entonces que el lehendakari se haya adelantado a trasladar al jefe del estado una propuesta bastante perfilada de lo que debiera ser ese nuevo estatus para euskadi

en este foro no me ha escuchado hablar de las cuestiones que dice que yo he planteado a don felipe sexto de verdad que no me ha escuchado hablar hasta este momento de estas cuestiones

en cualquier caso se lo he dicho antes al señor urizar también en la pregunta que me ha formulado yo sé muy bien cuál es el papel que le corresponde a don felipe sexto y cuál es el que me corresponde a mí al margen de lo que puedan ser la traslación que los medios de comunicación o determinados medios de comunicación hagan de si yo he pedido o he dejado de pedir yo sé muy bien cuál es la función

mire y como usted bien sabe el lehendakari es el representante del estado en la comunidad autónoma vasca se lo he dicho también al señor urizar y cuando soy convocado a esa reunión

que siempre he defendido y he practicado también porque me interesa la situación del estado del estado en su conjunto me interesan los planteamientos para la reforma constitucional o el nuevo modelo de estado que está en boca de todos precisamente para ese proyecto de reforma y para ese nuevo modelo he podido plantear el método de trabajo que aquí

y yo especialmente diálogo negociación acuerdo y ratificación porque considero que es necesario construir desde la base desde el diálogo

por ejemplo la reforma constitucional refrendada no es un fin en sí mismo no es un fin en sí mismo para mí

tras un diálogo tras una negociación tras un acuerdo entre todos los partidos políticos

es cierto que cité los principios que usted menciona y tuve ocasión de exponer la razón el estatuto de gernika se ha dicho durante toda esta historia

que ha sido incumplido no le parece a usted señor pastor que las consecuencias de este

una imposición no le parece a usted que los principios de respeto de no subordinación de bilateralidad efectiva

son la garantía necesaria para una relación constructiva y leal fundamentada en el pacto de todas formas me asombra su asombro usted escuchó mi propuesta en esta tribuna en sucesivas ocasiones siendo candidato

ha trascendido a la prensa no es algo que nos hayamos inventado los socialistas es algo que parece ser que sale de la propia lehendakaritza y que traslada lo que usted manifestó

sino de ese proyecto de nuevo estatus y podemos intuir las aspiraciones de su partido aunque la verdad sea difícil aclararse sobre sus objetivos reales y especialmente sobre cómo pretenden alcanzarlos pero usted señor lehendakari

como máximo representante de euskadi no como dirigente del pnv déjele ese papel al presidente de su partido que para eso tienen ustedes la bicefalia porque sí trasladó al rey la posición que se ha publicado

actuó más como representante de su partido que como lehendakari porque los contenidos recogidos en los medios sobre ese llamado nuevo estatus político

no los que se puedan atribuir a este parlamento o al común denominador de los vascos porque esos contenidos

no se han aprobado no se han estudiado en esta cámara a día de hoy que yo conozca le recuerdo que cuando otras veces le hemos pedido concreciones sobre el asunto ha respondido reiteradamente eso sí en esta tribuna que hay que esperar

la responsabilidad de alcanzar un acuerdo y un consenso amplio y no me diga que conceptos como ejercicio de la voluntad de unión respeto y no subordinación

con esa expresión usted pone contenidos condiciones y límites muy precisos que condicionan el marco que en teoría está aún sin definir y sin debatir

como lehendakari actúe como tal como lehendakari y si usted tiene ya una idea precisa como parece de cómo debe ser ese nuevo estatus político

ni a los comparecientes para aportar su conocimiento o experiencia presente ya su proyecto si lo tiene hágalo

señor pastor no es el estatuto de autonomía de gernika el del año mil novecientos setenta y nueve merecedor de un reconocimiento de su singularidad no es el estatuto de autonomía de gernika de mil novecientos setenta y nueve de un reconocimiento de la necesidad de una bilateralidad efectiva ante lo que ha sido la práctica sucesiva de los gobiernos españoles también del partido socialista obrero español de incumplirlo de eso estamos hablando señor pastor

el nuevo estatus que salga aquí ojalá acordado entre las formaciones políticas y digo también ojalá entre las formaciones nacionalistas vascas y no nacionalistas vascas y que pueda ser

superponiéndome a lo que es el debate del parlamento vasco estoy basándome en lo que ha sido el ejercicio por parte también del partido socialista de euskadi
de lo que es el estatuto de autonomía eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

el acuerdo estratégico alcanzado por euskaltel con zte como lo han expresado empresarios cumplen e incluso superan todos los requisitos planteados por este gobierno recordando que euskaltel es una empresa privada gracias a este acuerdo

de alguna forma quien va a dar servicio a todos esos operadores del sur de europa prevé crear nuevos puestos de trabajo cualificado

por otra parte tendrá su sede fiscal aquí en la comunidad autónoma y tributará sus impuestos generando riqueza para este país el acuerdo es de diez años de duración

los que van a pasar a formar parte de zte el mantenimiento del empleo de las condiciones laborales actuales

de su antigüedad y mantenimiento del puesto de trabajo en el mismo parque tecnológico de zamudio por tanto todos esos requisitos de mantenimiento tanto

como del mantenimiento de la propia empresa se cumplen en este caso y permiten a euskaltel abrir un camino que es estrictamente necesario para continuar su trabajo eskerrik asko eskerrik asko

parecido términos en otra ocasión se puede decir que no había nada que hacer pero cuando ante las malas noticias se dicen que son buenas noticias pues eso ya resulta más preocupante

los trabajadores de euskaltel sobre el acuerdo hay dos sindicatos ela y comisiones ela dice supone un proceso de externalización que afianza el desmantelamiento de euskaltel y a futuro significará una pérdida de derechos laborales y comisiones obreras

no se acertaron con otras series de decisiones estratégicas hay una trayectoria de la que euskaltel como empresa es rehén son decisiones que han lastrado a la compañía y nos han abocado hasta este acuerdo con zte lo cierto es que los últimos años los activos de este país se están regalando

repito garantía de mantenimiento del empleo garantía de mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores garantía de mantenimiento de la antigüedad

en los parques tecnológicos luego cambian las condiciones laborales y pérdida

que estemos hablando de si nos gusta o no nos gusta que una inversión extranjera

se implante aquí y crezca el número de puestos de trabajo y haga crecer todo el tejido productivo alrededor de las telecomunicaciones nosotros creemos que es importante eskerrik asko

que en virtud de lo dispuesto en los artículos veintinueve de la ley uno barra dos mil doce de creación de la autoridad vasca de la competencia

de la ley quince barra dos mil siete de defensa de la competencia todas las personas que tomen parte en la incoación instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores de competencia al igual que toda persona que por razón de su cargo o profesión tuvieran conocimiento del contenido del procedimiento

por tanto no podemos más que actuar según lo estipulado en la normativa vigente en lo que respecta a la segunda de las cuestiones es decir a las bases del nuevo procedimiento de contratación para el suministro de comidas a centros públicos dependientes del departamento de educación política lingüística y cultura cabe señalar que existe en la actualidad un acuerdo en vigor suscrito en dos mil once

así como los servicios afines a este suministro para centros públicos con comedores de gestión directa dependientes del departamento dicho acuerdo marco fue suscrito en el año dos mil once y preveía una vigencia de cuatro cursos escolares dos mil once dos mil doce

por lo tanto dicho acuerdo permanece en vigor durante todo este curso de lo que se deriva la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de contratación cuya ejecución se inicie en el curso dos mil quince dos mil dieciséis beraz bigarren gaiari dagokionez hau da

esta administración se encuentra en la actualidad definiendo las condiciones requisitos y característica

así como en el pliego de cláusulas administrativas que vaya a regir el procedimiento contractual como todos ustedes saben es nuestro deber garantizar que la contratación

publicidad y transparencia en los procedimientos no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos salvaguarda de la libre competencia y la elección de la oferta más ventajosa todos ellos constituyen principios de carácter transversal que informan las actuaciones de las administraciones públicas en los procesos de contratación

ejecución en este primer momento procede definir la voluntad de la administración en aras a un procedimiento que garantice la adecuación de la prestación al interés público que se pretende

somos plenamente conscientes de la importancia de este procedimiento esto es de la importancia de unas buenas bases que además de garantizar obviamente el marco de legalidad garantice un servicio de calidad a nuestros alumnos y alumnos que son el centro de nuestro sistema educativa

la incorporación de criterios de estas características en los pliegos contractuales no es una cuestión baladí sino que requiere de un análisis en profundidad

que es el que estamos llevando a cabo en la actualidad en este sentido ha de recordarse que tanto la normativa europea como la normativa específica en materia de contratación

a efectos de evitar limitaciones de la concurrencia eskerrik asko

presidenta consejero en la sesión del siete de noviembre el parlamento vasco analizó la grave situación por la que pasa en estos momentos la sociedad vasca debido al crecimiento de la pobreza y el riesgo de exclusión social entre otras cuestiones el pleno acordó a iniciativa socialista que con la intención de reducir al máximos

el gobierno vasco debe elaborar en tres meses el plan específico para el refuerzo de la inspección de trabajo

orientados a la lucha contra el empleo sumergido las jornadas abusivas los falsos autónomos y cualquier otro tipo de vulneración de la legalidad

ha denunciado que el gobierno vasco está desmantelando la inspección de trabajo en el país vasco que cuenta con menos efectivos de los que había antes de que el país vasco asumiera

se da la circunstancia que desde que se aprobó la relación de puestos de trabajo a finales del dos mil trece es posible mediante concursos cubrir la cobertura de todas las vacantes que se han producido desde el traspaso competencial según datos que figuran en el decreto ciento treinta y ocho de veintiocho

de traspaso de funciones a la comunidad autónoma del país vasco de la inspección de trabajo el uno de enero del dos mil doce fueron traspasados diecinueve inspectores en bizkaia diez en gipuzkoa y seis en álava y además

quince subinspectores la situación no es tan grave como se planteaba por la asociación de inspectores de trabajo

y tres vacantes en gipuzkoa las dos de álava no tienen problema porque tienen reserva de plazas y una está cubierta por comisión de servicios desde hace tiempo y la otra se va a cubrir

seis plazas vacantes de inspectores de trabajo que es importante cubrir a la mayor brevedad posible por ello consejero le formulo la siguiente pregunta

que existían en el momento de la transferencia eskerrik asko

sánchez anderea a este respecto le puedo contestar que la plantilla es

la misma no se ha reducido en absoluto y que si hay plazas vacantes sin cubrir

la cobertura de esas plazas se realizan a través de la administración general del estado con respecto al futuro estamos diseñando un plan específico para el refuerzo de la inspección de trabajo que prevé dos tipos de medidas

por lo tanto lejos de desmantelar estamos reforzando la inspección de trabajo en euskadi eskerrik asko aburto jauna

consejero es importante en un momento de crisis con una fuerte repercusión de la misma sobre la inspección de trabajo y siendo este cuerpo el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa vigente procurar a la mayor brevedad posible cubrir al menos todas las vacantes existentes en la actualidad en la inspección de trabajo del país vasco que antes he señalado por eso es importante

la inclusión de esas plazas vacantes en concurso público ya que tal como señala el anexo seis del acuerdo complementario uno

de la inspección de trabajo anexo referente a ingresos y provisión de puestos tiene que hacer

no ha existido concursos y todavía están a tiempo para solicitarlos

pidan dado el tiempo transcurrido y que este va a ser el primer concurso que se realizará desde la transferencia la cobertura como mínimo de todas las vacantes existentes y voy más allá

por superar el número de plazas de inspectores trasferidos porque es de vital importancia

y cumplir así también el mandato que se aprobó el siete de noviembre en este parlamento vasco donde se pedía al gobierno vasco que elabore en tres meses un plan específico

orientados a la lucha del empleo sumergido las jornadas abusivas los falsos autónomos y cualquier otro tipo de vulneración de la legalidad nada más y muchas gracias

señora sánchez la plantilla transferida está integrada por el subdirector por cinco puestos en la unidad central noventa y nueve puestos en las inspecciones territoriales de los cuales cincuenta y tres son puestos de inspector y subinspector y nuestro propósito es

elevarla en seis más como conté en este parlamento esa pretensión está ya trasladada a la dirección de función pública para poner los procedimientos en marcha

seis exactamente pero al tratarse de personal de cuerpos nacionales las vacantes no pueden ser cubiertas de manera autónoma por nuestra administración ya que no existe

del personal inspector interino y es preciso esperar a la convocatoria de esos concursos de traslados o de plazas de nuevo ingreso en el sistema de inspección de trabajo y seguridad social

para lograr cubrir las vacantes de manera temporal en tanto se articulan los procedimientos de cobertura definitiva de las vacantes señalar en este sentido que los procedimientos de cobertura de vacantes y de situaciones administrativas

es coincidente con el que se venía utilizando antes de la misma y es común en todo el estado al tratarse de un cuerpo como decía de carácter nacional de hecho el uno de diciembre se incorporará una inspectora de trabajo y seguridad social y el uno de enero otra más

administración general del estado a lo que hay que añadir que se han convocado el resto de vacantes existentes para su cobertura en el concurso general de traslados cuya gestión corresponde a la administración general del estado y que se espera se desarrolle en los próximos meses

a inspectores y a subinspectores de empleo quedarían cubiertas a la espera de la ampliación de las plazas antes referidas por lo tanto por un lado cobertura a través del concurso

y por otro lado ampliación de seis plazas más que habría que cubrir con nuevas comisiones de servicios o en su caso esperar a nuevos concursos así mismo medidas de refuerzo de la actividad

en el incremento de las intervenciones programadas en esas materias que a usted y a mí también me preocupan formulando una estrategia coherente de fiscalización del cumplimiento de las normas y de los derechos laborales estamos diseñando y actuando en campañas especificas dentro del marco de la estrategia

como las de detección del fraude en la contratación temporal y la de incumplimientos en materia salarial nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna